daude gorritzekoa da ochenta y uno iniciativas desde el inicio de la legislatura y ya no se trata de debatir se trata de que el gobierno

una y otra vez le estamos pidiendo de ahí de nuestra enmienda de transacción de la que hemos firmado entre eh bildu y el grupo socialista hablábamos de problemas sin resolver y hay varios que se repiten año a año desde que se presentan las solicitudes de aes en los servicios sociales de base hasta que las personas las familias que lo necesitan empiezan a recibir esas cuantías pasan meses porque desde que el gobierno vasco publica la orden que regula estas ayudas hasta que transfiere las cantidades que corresponde a cada ayuntamiento para empezar a pagarlas

horrekin ez da ezer konpontzen betiko leloa el gobierno vasco no puede limitarse a decir que el dinero no llega o tal y como nos plantea el partido nacionalista vasco en su enmienda a la totalidad que si pueden aumentarán

nos parece una actuación irresponsable por parte del gobierno porque dinero hay la cuestión es si hay o no hay voluntad política

en el que todos los grupos hemos estado de acuerdo pero mientras tanto le instamos a que tome las medidas que una y otra vez aquí le hemos repetido no las voy a repetir porque creemos que ya han sido suficientemente

portavoces anteriores tenemos que recordarles que todos los grupos políticos representados en el ayuntamiento de gasteiz es la tercera vez que lo décimos firmaron un acuerdo muy parecido a este el treinta y uno de julio

a la falta de compromiso de su gobierno el alcalde de gasteiz del pnv ha asegurado que pagará las aes desde enero del próximo año y que atenderá con recursos propios a las solicitudes que se presenten cuando se acabe el presupuesto

una vez más el partido nacionalista vasco deja claro que está de acuerdo con lo que hoy aquí hemos firmado siempre y cuando sea fuera del parlamento betiko

menos para confeccionar los presupuestos del año anterior se mantuvo la misma cantidad para las aes diecisiete millónes trescientos mil euros presupuesto año dos mil catorce veinte millónes quinientos mil euros para aes año veintidós millónes de euros en presupuestos para ayudas de emergencia social la apuesta del gobierno por las personas por aquellas que peor lo están pasando es clara y los datos lo avalan talde proposatzaileak

debate que hemos tenido relacionado con este tema por tres puntos que voy a mencionar telegráficamente uno fecha de aprobación

gobierno socialista con la inestimable ayuda del partido popular dos es

la cuantía aplicable en cada caso particular deberá ser minorada por el ayuntamiento competente teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestarias existentes y tres porque es un mero hecho de justicia

ha de ser justo con las personas que se puedan encontrar con una situación de emergencia tanto en enero como en diciembre por lo tanto los ayuntamientos tienen esa obligación de

por lo tanto pongamos en valor la normativa actual en su totalidad porque este último artículo del decreto regulador de aes también

el compromiso de euzko abertzaleak y del gobierno vasco con la ley de garantía de ingresos y para la inclusión social es firme

garantiza la dignidad de las personas que peor lo están pasando aquellas que están en riesgo de exclusión como hemos dicho en múltiples ocasiones y gracias a la solidaridad de la sociedad vasca

mantener el sistema de protección social es una prioridad para el gobierno vasco que se dedica a garantizar que este apoyo llegue a las familias que lo necesitan

el gobierno vasco está haciendo un esfuerzo muy importante por mantener la cobertura regulada en la ley

nos parecen injustas las manifestaciones realizadas por los portavoces de otros grupos tratando de presentar a un gobierno despreocupado con las necesidades básicas de los y las ciudadanas y acusándole de falta de voluntad política sobre todo porque saben que no es cierto este gobierno está preocupado por todas las personas

las personas no pueden decir lo mismo todos los portavoces azaldutako guztiagatik eta koherenteak izanda orain arte

murriztu beharko du dauden aurrekontuen baliabideak kontutan hartuta sorprende la postura del partido socialista aceptando los puntos de la iniciativa original porque señora sarasua no creo que tenga que recordarle que los presupuestos fueron aprobados con los votos del partido socialista por lo tanto a nuestro juicio resulta cuando menos incongruente su actitud

respecto al punto tercero de la iniciativa del partido popular como venimos repitiendo en los debates de finales de año de esta legislatura relacionados con las aes ya tendremos tiempo

de hablar de los presupuestos de dos mil dieciséis cuando se presente el anteproyecto en el parlamento respecto a la enmienda de adición del partido socialista decirle que ya tratamos este tema en marzo como usted bien ha explicado también y salió con amplio consenso

y el compromiso del gobierno en traer a la comisión de políticas sociales la evaluación y estudio de las nuevas situaciones así como los cambios que ello conllevaría todo ello

todavía no ha transcurrido dicho plazo y esa enmienda esa transaccional fue aprobada con los votos también de este grupo por lo tanto tampoco íbamos a apoyar dicha enmienda de adición porque el gobierno ya está trabajando

los ajustes a realizar previamente a su aprobación definitiva dejemos

a que se cumpla el plazo dado por el propio parlamento para que realice dicho trabajo antes de volverle a exigir en el mismo sentido bilduren zuzenketari buruz

estábamos de acuerdo con la iniciativa original estábamos de acuerdo y estamos de acuerdo con las enmiendas que se han presentado por parte de los grupos que han firmado finalmente esta transaccional

voy a reiterar cuáles son los argumentos de upyd se ha hablado de

yo creo que lo que se ha demostrado en los últimos tiempos es que el gobierno vasco no ha tenido voluntad política de cumplir estos mandatos parlamentarios siempre ha planteado que no tenía dinero suficiente para cumplir esos mandatos parlamentarios nosotros efectivamente sí pensamos que es cuestión de voluntad política y hacemos un llamamiento por lo tanto al gobierno para que cumpla esta transaccional

algo que incluso podría ser más importante hacemos un llamamiento a todos los grupos de este parlamento para que no aprueben los presupuestos del ejercicio dos mil dieciséis en el caso de que el gobierno vasco no cumpla lo que este parlamento le está exigiendo en relación a las ayudas de emergencia social eso serían no palabras está bien firmar enmiendas transaccionales pero los diferentes grupos tenemos la responsabilidad de aprobar o no determinados presupuestos y los presupuestos del gobierno vasco por lo tanto hago un llamamiento a los grupos políticos de esta cámara

en el caso de que no incluyan las partidas necesarias en las ayudas de emergencia social para cubrir toda la demanda de la sociedad vasca nada más y muchas gracias

legealdi honetan mantendutako jarrera ez dela aurreko legealdian mantendutako jarrera y otra cosa que vemos claramente es que usted hoy aquí

cuando el alcalde de vitoria parece ser de vitoria gasteiz ha puesto mucho empeño en lograr un acuerdo por unanimidad en relación a la financiación de las ayudas de emergencias social instando al gobierno vasco a que se financien esas ayudas y ustedes aquí obviamente no

ese acuerdo el gobierno vasco no está cubriendo toda la demanda de ayudas de emergencia social no se está cubriendo se están disparando las solicitudes y no se están cubriendo

cubrir de manera suficiente todas las demandas de ayudas de emergencia social y además establecía una novedad que era que no hubiera límite presupuestario para ello esa es la obligación del gobierno el gobierno tiene que cumplir la ley no son declaraciones mías son las declaraciones de la señora eider mendoza actualmente presidenta de las juntas generales de gipuzkoa

portavoz de estas cuestiones en materia social hasta que dejó el escaño en el parlamento por lo tanto

haciendo este discurso por lo tanto credibilidad ninguna credibilidad cuando usted hace aquí

serán el gobierno de la palabrería pero el gobierno de las personas no pueden ser cuando luego ustedes cuando llegan iniciativas concretas que tienen que ver con la vida de las personas con mejorar la calidad de vida de las personas con resolver los problemas de las personas

y que ustedes además cuando tramitó esta ley

dicha previsión a la que antes hacía referencia por lo tanto

hoy como se ha dicho aquí en reiteradas ocasiones es la falta de voluntad nuevamente de este gobierno en asumir sus responsabilidades en relación con las personas de todas maneras

volveremos a plantear como grupo parlamentario una enmienda de incremento de esa

del guindo y sobre todo ya digo que me parece muy incoherente esa posición

las afirmaciones que realizaba en la anterior legislatura y sobre todo cuando alcaldes suyos les están pidiendo que pongan más dinero por lo tanto parece ser que ni siquiera ya a sus alcaldes les hacen caso no ya a los ciudadanos vascos sino que no siquiera al reciente

no le hacen mucho caso por lo menos en esta cuestión a pesar de tener un mandato por unanimidad

andrea señora arregi salgo por lo que usted ha dicho

antes que descalificar es verdad que hay muchos debates sobre la financiación de las ayudas de emergencia social pero es que no solo

tenemos que tener en cuenta lo que la propia ley de garantía de ingresos y para la inclusión social dice literalmente en su artículo

se pueden consignar anualmente en los presupuestos generales de la comunidad autónoma de euskadi los recursos económicos suficientes para la financiación de las cuantías de las prestaciones económicas reguladas

por lo tanto el gobierno vasco debe garantizar la financiación de las ayudas de emergencia social y de manera coyuntural aún con más razón en una situación como la actual y no se puede tomar como excusa falta de crédito y además he de decir que los presupuestos evidentemente que están aprobados con el

evidentemente porque nosotros somos responsables y corresponsables y hay que reconocer y agradecer el trabajo que también estamos haciendo

pero también he de decir que ustedes saben que esa partida es ampliable esa partida es ampliable porque cómo podemos predecir a primeros de año

para eso se presentan los informes trimestrales desde los ayuntamientos y hay que venir aquí a argumentar

y sabe lo que le digo que yo creo en actitudes más que en palabras porque aquí podemos decir pero hay que hacer y usted ha dado los datos de gobierno nacionalista yo si quiere le recuerdo lo que hizo el gobierno socialista y está en la hemeroteca y le puedo decir que lo tengo aquí además lo traía que en el dos mil nueve

y a la prestación complementaria de vivienda eran treinta y cuatro millónes y medio y que el gobierno socialista sí procedió a ampliar por dos años consecutivos

que ustedes planteaban en este parlamento y que antes decía justo lo que ahora no quieren decir

en las sesiones de este parlamento y bueno en cuanto al decreto efectivamente si yo lo que he explicado es que ese decreto

está ahí pero bueno también hay constantes incumplimientos del gobierno estamos hablando de las ayudas de emergencia social y yo mire he traído

lo que dice porque es el programa del gobierno vasco al que ustedes sujetan dice las personas son nuestro eje de actuación el que da sentido a nuestro gobierno pues que lo demuestren día a día prestarán especial atención a los grupos más vulnerables sin permitir que nadie se quede atrás qué significa

y el compromiso del lehendakari del gobierno vasco es con las personas ese es el lema y bueno no voy a repetir las palabras de eider mendoza porque ya las ha dicho la señora garrido pero desde luego

decían una cosa y ahora dicen otra y por lo tanto yo creo señora arregi que bueno usted quiera o no quiera plantear aquí sus argumentos

ante una votación que por cierto es una propuesta que ustedes hacían y que el alcalde de vitoria también la está haciendo no sé cuando usted habla de incoherencia pues hombre yo creo que también se tienen que mirar un poco en sus propias carnes y en su propia casa porque si el alcalde de vitoria

imagínense el resto de alcaldes lo que están haciendo que por cierto son plurales maravillas y complementando a duras penas para poder sacar adelante a muchas familias

que son los que realmente interesa y los que nos debieran interesar a todos los grupos por mi parte nada más y muchas gracias eskerrik asko sarasua anderea eh bildu taldearen ordezkaria blanco anderea zurea da hitza

una de veintidós cinco millónes de euros más y nos hablaba del esfuerzo que hacía el gobierno vasco en este caso

cinco millónes más ha puesto el gobierno vasco los ayuntamientos lo ha dicho otra portavoz ocho millónes

y ha vuelto a hablar de minorar sí se recoge en la orden tiene usted razón

una cosa le voy a decir si el dineroles llegase seguramente no tendrían que minorar

que le tengo que decir minoran a su criterio nadie les dice cómo tienen que minorar minoran a su criterio y uno de los argumentos que usted ha dado

que las personas o las unidades convivenciales que soliciten ayudas de emergencia social en diciembre

lo comparto sabe usted que un ayuntamiento gobernado por el partido nacionalista vasco

poner número como en la carnicería y cuando los números se agotaban

por tanto los que presentaban en abril mayo junio hasta diciembre no recibían aes

entonces es otra responsabilidad que recae sobre los ayuntamientos

a nosotras y a nosotros no nos lo tiene que explicar explíqueselo a otros alcaldes y alcaldesas y al señor urtaran que parece que no conoce que tiene que minorar hablan de voluntad de que les acusamos una y otra vez de que no tienen voluntad política claro que no tienen voluntad política si hay dinero pero si en los presupuestos cuando metemos las enmiendas les décimos cuánto dinero y de dónde hay que sacarlo

tienen el dinero de dónde sacar y votan en contra eso qué es

falta de voluntad política sí una y otra vez nos repetimos raca raca la misma matraca unos grupos

ochenta y uno iniciativas hasta que el gobierno vasco no dé los pasos necesarios para que esta situación cambie

entonces a ver si de una vez por todas tiene en cuenta lo que aquí hoy se aprueba besterik ez eskerrik asko

eta ez du betetzen dekretuak esaten duena y quizás si el señor maroto cuando era alcalde

en la situación en la que se encuentra en este momento nos hablaba de credibilidad de este

gobierno sobre la credibilidad que ponía en duda la credibilidad del gobierno pues mire señora garrido

los y las ciudadanas con sus votos así que no le veo a usted muy legitimada

usted decía que antes se aprobó con unanimidad y que ahora no eso no es cierto y tanto que ha estado hablando del señor urtaran entiendo que le pueda escocer

de gasteiz y que ha firmado y que ha apoyado esa moción el señor urtaran ha sido coherente y lo ha firmado cuando estaba en la oposición y cuando está gobernando el ayuntamiento de gasteiz pero señora sarasua no pueden decir lo mismo

encargada de este departamento del departamento de políticas sociales del gobierno vasco los concejales del partido socialista no

por lo tanto hablando de congruencias coherencias etcétera aplíquese el cuento y señora garrido no se preocupe que el señor urtaran

pero no va a venir o no creo que venga nadie del partido nacionalista vasco a enmendarle la plana

yo lo que he venido a decir es que la ley hay que contemplarla en su totalidad y el decreto regulador de las aes también es parte de la normativa reguladora

es claro y exige ese imperativo de que hay que reducir

a todas las solicitudes de ayudas me decía la señora blanco

hablaba de cómo se venían haciendo dichas disminuciones etcétera

en muchísimas ocasiones y siempre que hemos debatido y el gobierno también dispuestos a mejorar y a sentarnos a hablar de lo que sea menester

se acordó en este parlamento tienen carácter subvencional y estamos dispuestos a sentarnos pero siempre fuera

de periodos electorales porque creo que no hacen ningún favor a lo que de verdad y en el fondo

la mejor protección para las personas que peor lo están pasando

que a pesar de que parezca que son insuficientes las aes y que la señora blanco hablaba de cinco millónes

esas cantidades son a añadir a la suma que el gobierno

y para pcv que estas sí que son derecho subjetivo y en la medida que se van acabando

es obligatorio por ley implementar dichas cantidades por lo tanto hablemos

seriedad porque evidentemente el esfuerzo en materia de protección

muy importante y así seguirá siendo besterik ez mila esker eskerrik asko

el gobierno vasco remitió al parlamento la memoria sobre el reparto y gasto en publicidad institucional del dos mil catorce reflejando nuevamente un innegable trato de favor al grupo noticias respecto de medios de comunicación

el año anterior el trato de favor hacia el grupo noticias es incuestionable

mucho más dinero que el resto de medios que operan en euskadi el lehendakari en julio del dos mil catorce en comparecencia ante la diputación permanente se comprometió a corregir ese trato puesto ya de manifiesto durante el ejercicio dos mil trece en aquella comparecencia reconoció que no estaba satisfecho de cómo se había producido el reparto de publicidad durante el año dos mil trece extremo denunciado por todos los grupos de la oposición

en el pleno anterior por su portavoz y consejero de administración pública y justicia el lehendakari

reconoció que se habían producido errores y que había aspectos que se debían mejorar entonces lo que se refiere a las formas denunciadas incluso judicialmente por upyd

denunciadas políticamente por todos los grupos de este parlamento excepto por el grupo nacionalistas vascos unos meses después en octubre este parlamento aprobó por amplia mayoría una proposición no de ley en la que se censuraba la utilización de fondos públicos

afines al gobierno y se le instaba a limitar al máximo la contratación de publicidad y que las campañas se ajusten a ciertos principios entre otros la no

se observa se confirma que las cifras siguen siendo muy favorables para el grupo de comunicación más afín al nacionalismo vasco

gobierno vasco en respuesta parlamentaria el lehendakari se escuda en la comisión de publicidad y llega a decir que se aplican criterios objetivos criterios que sin embargo no explica y llega a decir que el gobierno realiza su comunicación atendiendo a los criterios de profesionalidad equidad y transparencia

y olvidando otros criterios fundamentales como la no discriminación o la proporcionalidad entre la inversión y la difusión es decir la rentabilidad de lo que gasta el gobierno vasco en publicidad lo cierto es que el tema de la publicidad institucional en principio supuestamente una cuestión menor en el vastísimo catalogo de temas que abarca la gestión de un gobierno sobre todo si se hace bien se ha convertido sin embargo en esta legislatura

y lo ha sido por la utilización ilegal y torticera

y por la descarada utilización del dinero público a favor de sus amigos

no critican ni censuran lo que hace el gobierno vasco cabe recordar por cierto que sigue su curso la denuncia interpuesta por upyd contra el gobierno vasco por contratar ilegalmente publicidad simulada

extraordinariamente graves esa denuncia sigue adelante sigue adelante lenta pero segura la justicia general suele ser lenta pero en todo caso esperamos que

más pronto que tarde hemos debatido sobre este asunto ya varias veces incluso se tuvo que convocar una diputación permanente en julio del año pasado para que compareciera el lehendakari en esa sesión recordemos que el señor urkullu reconoció que se habían hecho cosas mal

el rumbo en octubre del año pasado hace ahora un año volvió el tema a este salón de plenos

un pronunciamiento de todos los grupos de la oposición en el que se denunciaba de nuevo el trato de favor al grupo noticias el más cercano ideológica y empresarialmente al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco le recuerdo el punto quinto de aquel acuerdo el parlamento vasco censura

lo que representa una financiación ilegal de los mismos y fomenta una competencia desleal en el sector pero nos volvemos a encontrar con la misma historia este año a pesar de los golpes en el pecho del lehendakari y de la promesa

a llegar los datos relativos a la publicidad del año dos mil catorce nos encontramos otra vez con la misma situación favoritismo descarado hacia el grupo amigo

que favorece las tesis de su partido político y para demostrarlo una vez más tenemos que recurrir a las cifras el grupo vocento recibió algo más de novecientos sesenta mil euros en publicidad y el grupo noticias trescientos nueve mil es decir el triple

según el ojd respecto al segundo ni qué decir tiene que esta situación se reproduce también respecto al resto de medios y por ejemplo

mucho mayor que otros medios de comunicación escritos y que otros periódicos hay que reconocer que en medios escritos se ha mejorado algo respecto

de su capa un sayo y favoreciendo descaradamente a onda vasca esta emisora es la última en cuanto a difusión de las radios convencionales vascas reduciendo incluso su audiencia respecto al año anterior según datos de cies tiene cincuenta y cinco mil oyentes le supera la ser cuarenta principales con trescientos cincuenta mil el grupo e i te be

grupo nervión y radio nacional pero aquí se produce el milagro de la objetividad y la equidad en una respuesta del lehendakari al señor pastor del grupo socialista el lehendakari dice textualmente

objetivo y más adelante añade que el gobierno realiza su comunicación atendiendo a los criterios de profesionalidad equidad y transparencia porque tendremos que considerar que sea un milagro que quien menos oyentes tiene ingrese más dinero que el tercero o el cuarto o el quinto en volumen de audiencia

a todos los medios de comunicación a los públicos y a los privados

que son aquellos que tienen más afinidad con el gobierno y con el partido nacionalista vasco tampoco parece muy equitativo que los ingresos de onda vasca sea la mitad que los de la ser

los oyentes ni que obtenga poco menos de la mitad de dinero que las emisoras del grupo e i te be teniendo siete coma cinco veces menos oyentes este

lo hacen todos los departamentos del gobierno vasco aunque algunos de forma más descarada algunos son especialmente favorables a favorecer al grupo noticias como el departamento de empleo que da más publicidad al grupo noticias que al grupo vocento mientras que seguridad medio ambiente

de ejemplares vendidos por cierto las cifras del primer cuatrimestre de dos mil quince parece que consolidan la tendencia a favorecer

el triple que onda cero aunque esta le duplica en oyentes y el grupo nervión recibe solo el diez por ciento de lo que el gobierno vasco se ha gastado en publicidad en onda vasca aunque también le supera en oyentes es que son proporciones insultantes ciertamente para que un lehendakari diga por escrito sin ruborizarse en una respuesta parlamentaria que la política del gobierno vasco se hace

es un auténtico escándalo y llama la atención la impunidad con la que funciona este gobierno y el partido nacionalista vasco por mucho que se haya censurado esta actitud en los últimos tiempos en los últimos meses en el último año lo cierto es que el gobierno vasco y el partido nacionalista vasco

impunidad sus propios documentos porque los datos que hemos

delatándolos están demostrando su descarado favoritismo hacia un grupo de comunicación al que están

y les da igual como decía que este parlamento les haya censurado ya varias veces ese comportamiento lo siguen haciendo en los medios de comunicación siguen

y eso es una forma de corrupción política ustedes que tan amigos son de hablar de manos limpias de comisiones éticas y de grandes palabras para criticar a otros

están utilizando el dinero de la sociedad vasca para financiar a determinados medios afines y esto es una vergüenza y esto tiene un nombre esto es corrupción como se llame en nuestra opinión esto es corrupción porque están destinando recursos del erario público para favorecer la cuenta de resultados de unos medios privados de unos medios de comunicación afines al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco esto es una mala praxis democrática

iniciativa proponemos que este parlamento censure la utilización de fondos públicos para favorecer a determinados medios y grupos de comunicación afines al gobierno vasco y proponemos instar al gobierno vasco a limitar al máximo la contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación que no se encuadren en las campañas de interés general y que en todo caso deberán ajustarse a los principios de transparencia

a la penetración de los medios de comunicación en la sociedad vasca esta es nuestra propuesta hay una enmienda planteada por eh bildu de dos puntos el primero de ellos lo compartimos viene a decir básicamente lo que les dice upyd en su iniciativa original

es buena idea esto de instar al gobierno vasco a traer una instrucción que recoja los criterios para el reparto de publicidad y el sistema para evaluar su aplicación pero no compartimos con la segunda parte del punto segundo de eh bildu cuando dice que dichos criterios deberán tener en cuenta

pero también el nivel de euskera que utilizan no estamos de acuerdo y por esto pues en fin no compartimos y pedimos al resto de grupos

para que voten a favor de la iniciativa original que creo que es más clara y va a lo que importa en este asunto censurar al gobierno vasco por la utilización en mi opinión fraudulenta del dinero público para beneficiar a determinados medios de comunicación si sale adelante si se aprueba habrá que pensar

no podemos aceptar que este parlamento apruebe determinados mandatos parlamentarios y que el gobierno vasco los incumpla todos espero en todo caso que hoy al menos
se apruebe esta iniciativa de upyd muchas gracias eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta muy brevemente porque cuando tuvimos la oportunidad de conocer la iniciativa presentada por el

lo primero que pensé es cómo abordamos esto porque ya lo hemos debatido en varias ocasiones lamentablemente porque es un tema que al final tampoco admite demasiada confrontación y demasiado debate porque parece lógico que lo que está bien está bien

y porque al final estamos hablando de algo que por un lado sí depende obviamente del cumplimiento de la ley de la norma que obliga a los gobiernos a las administraciones públicas a destinar el dinero público el dinero de todos de una manera concreta que además que

pero también depende de las voluntades y de cómo entiende uno el ejercicio del poder

desde las instituciones tiene que tomar decisiones relacionadas con el dinero público a dónde lo destina y cómo lo destina pero la realidad objetiva yo creo que todos coincidiremos en eso

es que este gobierno el gobierno de partido nacionalista vasco es un gobierno que está bajo sospecha en cuanto al buen y correcto uso del dinero público en materia de publicidad por el propio lehendakari el que reconoció también que se habían cometido errores y que había que rectificar por el lehendakari en sede parlamentaria ha habido pronunciamientos de esta cámara también en ese sentido pronunciamientos de lo que hemos censurado la mayoría de esta cámara ha censurado

del gobierno vasco en esta materia porque no en vano cabe recordar

se pagó publicidad enmascarándola como contenidos informativos esta práctica no se subscribió tan solo a un departamento del gobierno vasco sino que fue podíamos decir que casi transversal

y hay fundadas sospechas del trato a favor de determinados grupos de comunicación en detrimentos de otros y antes hacía mención expresa por un lado está el cumplimiento de ley y otro está la actitud

porque es importante sería importante más que importante sería necesario fundamental que todos y cada uno de los que tienen entre sus responsabilidad la administración del dinero público con carácter ejecutivo

es sagrado si se puede decir de esta manera y que no puede utilizarse de manera interesadamente para favorecer ni una opción política

los gobiernos tienen derecho incluso la obligación

de aquellas cosas que hacen y defienden lo que no tienen derecho

o darle un uso partidista interesado y el dinero público por lo tanto es

porque no debe responder a ningún interés

generales de una sociedad en este caso de la sociedad vasca y no contentos con estar bajo sospecha no contentos con haberse equivocado

no contentos con eso parece que el gobierno vasco no rectifica

y parece que nos obliga a esta cámara a hacer un nuevo pronunciamiento que censure esa actitud del gobierno vasco que entre otras cosas ha perdido no sé si alguna vez lo ha tenido

y es neutral nosotros por lo tanto aprobaremos

de upyd y esperamos que tenga el concurso y el acuerdo del resto de formaciones de la cámara muchas gracias eskerrik asko sémper jauna

gracias presidenta yo también intentaré ser breve porque esta no es la primera vez que este tema ha vuelto el pleno aunque es evidente que dada la nula presencia de miembros del gobierno

y hablamos de la gestión que este gobierno de la publicidad institucional a la que tanta atención dedica y su evidente sesgo

en esta ocasión no estamos hablando del escandaloso asunto de las inserciones publicitarias presentadas como si fueran información o si se quiere a la inversa del caso de las informaciones pagadas

entonces el gobierno a través de su consejero portavoz nos intentó atropellar la razón negando lo innegable y presentando esa conducta inaceptable

reconociendo esa mala práctica y diciendo que a él tampoco le gustaba

en lo cual a la luz de los datos que conocemos parece que no solo no ha hecho sino que ha incumplido el compromiso que asumió en este parlamento sin embargo y pese al mandato expreso de la mayoría de esta cámara ha continuado el escoramiento en la adjudicación de publicidad que pagamos a escote entre todos

y esto no es una valoración objetiva me van a disculpar ustedes que repita de los datos que ha dado el señor maneiro pero es que son datos concretos datos que este parlamentario consiguió después de insistir muchas veces a lehendakaritza

por empresas informativas y por departamentos el desglose evidencia un desequilibrio tremendamente llamativo entre lo que recibe los medios del grupo noticias y el resto a tenor de sus audiencias respectivas en el capítulo de prensa escrito el grupo noticias deia diario noticias de gipuzkoa noticias de álava

por campañas publicitarias anuncios y patrocinios esta cantidad supone una tercera parte de los ingresos de los diarios del grupo vocento el correo y diario vasco

pero resulta que estos últimos periódicos venden en los kioscos siete coma ocho veces más según los últimos datos oficiales de información y control de publicaciones

pero según la encuesta general de medios en el que sí están los tres diarios del grupo noticias estos dos últimos diarios del grupo vocento venden cuatro coma cuatro veces más que los diarios del grupo noticias tomando esos datos oficiales y esa desproporción es aún mayor si se comparan

ingresados por el grupo noticias con otros diarios como gara

esta misma pauta pero además corregida y aumentada se repite en el caso de las emisoras de radio las emisoras del grupo noticia onda vasca ingresan del gobierno por publicidad en el año dos mil catorce ciento noventa y dos mil quinientos noventa y cinco euros

o los cuarenta principales cuando esta cadena multiplica en euskadi por seis la audiencia de onda vasca

y si se compara con la cifra facturada por las emisoras de radio de e i te be onda vasca ingresa dos coma tres veces menos cuando estas radios multiplican por más de siete veces la audiencia

por otro lado esta misma emisora recibe del gobierno vasco por publicidad tres veces más que onda cero cuando esta cadena tiene en euskadi una audiencia superior

y esta misma pauta se repite con pequeñas variaciones en el apartado de los diarios digitales aunque aquí la cuantía de publicidad facturada es notablemente inferior y si revisamos el gasto por conserjerías y no son datos

nos encontramos con que el departamento de empleo asigna al grupo noticias una cantidad muy próxima

cuando la difusión de los periódicos de este grupo multiplica al menos por cuatro la de los diarios del grupo noticias

la propia lehendakaritza su facturación es de ciento cuarenta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y nueve euros para el grupo vocento frente a ochenta y dos mil para el grupo noticias exactamente

y los datos no engañan son datos y cifras aportados por el propio gobierno a este grupo no le convence que el gobierno nos repita una y otra vez cuando se le pregunta que el reparto de la publicidad institucional se hace atendiendo criterios de profesionalidad equidad y transparencia

de quienes la deciden no voy a cuestionarla pero sí me parece que la transparencia y la objetividad y sobre todo la equidad brillan por su ausencia y cuando uno pregona la transparencia los portales de transparencia de este gobierno eso no solo hay que decirlo hay que hacerlo verdad y en este caso desde luego

aceptamos que no es fácil conseguir una proporcionalidad exacta

y siempre a favor del mismo grupo de comunicación canta mucho ya demasiado exagerada como para no sospechar de lo que es en realidad un trato de favor interesado y un favoritismo especialmente denunciable por llevarse a cabo con dinero público

salen perjudicados y no valen aquí argumentos falaces porque no estamos hablando de ayudas públicas a los medios de comunicación en los que cabría modular la proporcionalidad y favorecer por distintas razones a unas empresas

la finalidad de la publicidad institucional no es financiar a los medios informativos sino garantizar

y promover a través de ella su participación en la vida pública en consecuencia si lo que se pretende es hacer llegar esa información a la ciudadanía el gasto publicitario del gobierno

aquí sí en proporción directa al número de lectores oyentes o televidentes con que cuenta cada uno de los medios sin que quepan otros criterios otra cosa distinta son las ayudas públicas a los medios de comunicación donde hay que ponderar otros aspectos

que corrija su política publicitaria que el lehendakari cumpla su palabra y cuando dice que no le gusta lo que se ha hecho que no lo siga haciendo como viene pasando y apoyamos la demanda general de que traiga a esta cámara unos criterios claros y objetivos para la contratación de la publicidad institucional que garantice la libre concurrencia de todos los medios en plano de igualdad

de acuerdo al criterio que hay que aplicar según la propia ley vasca que es la difusión que tenga cada uno de ellos eskerrik asko pastor jauna

sí gracias presidenta es ciertamente triste es penoso es penoso que hayamos tenido que traer otra vez este asunto al parlamento porque efectivamente el gobierno vasco incumple nuevamente los mandatos parlamentarios

tengamos que volver a traer asuntos ya debatidos y que tengamos que traer asuntos ya debatidos porque efectivamente pasa el tiempo no se corrigen los errores

sigue financiando de manera prioritaria

este es el asunto y a los datos efectivamente me remito y usted trata de justificar lo injustificable la realidad

evidencia claramente que este gobierno trata de manera especial y da un trato de favor evidente a un determinado grupo de comunicación que es ese grupo de comunicación afín al gobierno vasco y al partido nacionalista vasco y los datos están ahí y son

a la verdad no se puede mentir en este parlamento como ya hizo en su momento por cierto el señor erkoreka consecuencia de lo cual upyd trajo una iniciativa para denunciar ese comportamiento mire

interviene cuando hay temas digamos que son muy importantes

y cuando se debaten temas que son muy espinosos o bien cuando se debaten temas muy importantes y muy espinosos como este por eso su grupo le ha elegido a usted para que haga frente a este debate

en el pasado pero es igual quien mande el grupo parlamentario de los nacionalistas vascos intervenir en este debate los datos son evidentes en la cuerda floja a este gobierno se evidencia que se financia prioritariamente a un determinado medio de comunicación ahí están

objetivos usted trata de mezclar este asunto con la denuncia de upyd aunque son hechos distintos es una denuncia de upyd por determinada publicidad

y este es un asunto digamos que tiene relación pero que es distinto se trata de denunciar el trato de favor que este gobierno dispensa a un determinado

las cosas que ha dicho de la misma forma que fue o es una vergüenza

en el debate de octubre del año pasado cuando decía que los grupos que han presentado y suscrito esta proposición reniegan de la realidad es decir de los compromisos que adquirió el lehendakari siete de julio y esto nos parece inadmisible decía han hecho oídos sordos a todo lo que se ha dicho y a los compromisos vigentes lo cual no nos parece nada bien no quien no asume los compromisos es el propio lehendakari uno por encima de todos uno por encima de todos que no

prioritariamente a un determinado medio de comunicación eso es lo que básicamente se le pidió a este gobierno hace un año y es lo que sigue incumpliendo por eso es ciertamente triste escucharle a usted y su falta de argumentos es triste releer ahora la respuesta dada por parte del gobierno portavoz socialista es triste escuchar todo este tipo de cosas producen vergüenza ajena yo espero que esto no le salga gratis al partido nacionalista vasco en fin los criterios pueden ser distintos no pero desde luego hay uno o dos que son fundamentales

que es el de la proporcionalidad que es el de tener en cuenta la audiencia de determinadas radios y los lectores de determinados medios escritos eso es absolutamente indispensable porque como decía acertadamente el señor pastor el objetivo de la publicidad institucional es garantizar el derecho a la información de los ciudadanos y es esto algo que no busca en absoluto al gobierno vasco lo que busca permanentemente privilegiar a un determinado medio de comunicación yo no tengo nada en contra de ese medio de comunicación yo no quiero que a ningún medio de comunicación democrático se le trate mal lo que me parece inaceptable es que haya ese trato de favor clarísimo hacia un determinado medio de comunicación todos los sabemos ahí están los datos no tiene usted justificación este gobierno no tiene defensa y ciertamente

de este gobierno que a pesar de que se debatió este asunto hace un año a pesar de que se convocó nada menos que la diputación permanente a pesar de que incluso se debatió la posible censura

ustedes siguen en la misma línea porque todo les resbala todo les da igual les da igual lo que diga este parlamento piensan que están ustedes por encima del bien y del mal y vamos a seguir trayendo este asunto tantas veces como sea necesario un hecho extraordinariamente grave estamos hablando de la apropiación indebida de dinero público por parte del gobierno vasco para entregárselo a un determinado medio de comunicación afín al partido nacionalista vasco y al gobierno vasco me he explicado señor egibar esto es lo que básicamente se denuncia ha ocurrido esto viendo los datos es evidente que sí que la diputación foral de gipuzkoa se comporta de manera semejante beneficiando

en fin eso se puede discutir en las juntas generales de gipuzkoa o lo discute usted con el grupo eh bildu estamos hablando del comportamiento específico

y es evidente que hay una apropiación indebida de dinero público para entregárselo a determinados medios de comunicación afines al partido nacionalista vasco

uribe o salga usted señor egibar eskerrik asko maneiro jauna

gracias señora presidenta muy brevemente para compartir una reflexión en voz alta

de esto que estamos debatiendo tiene una explicación no voy a decir psicológica porque es una explicación política pero sí es una explicación muy sencilla

y si cuando un partido político gobierna durante muchos años durante casi siempre

cuando tiene un poder político muy extendido y ejecutivo puede acabar confundiendo las cosas se puede acabar creyendo ser un partido guía puede acabar creyendo que las instituciones son suyas o que puede hacer en las instituciones y con las instituciones casi lo que quiera

puede pensar que no hacer lo que quiera pero sí hacer aquello que es justo y que le beneficia yo creo que en buena medida es lo que ha sucedido en euskadi ante muchos años y lo que en buena medida también

que las instituciones le pertenecen por derecho natural o por derecho divino y que bueno pues que puede tomar decisiones en materia de publicidad siempre y cuando le beneficien aunque no sean justas ni ajustadas a derecho

los cálculos de haber cómo lo explico pero lo que es una realidad que debería hacerle pensar a este gobierno es que toda la oposición toda la oposición

los datos que hemos tenido oportunidad de conocer avalan esta tesis de una utilización no ajustada a derecho y desde luego a la ética política la utilización de dinero pública en materia de publicidad algo

pensar transparencia claridad

buen uso del dinero público que es al final como decir una buena gestión pública

y si ustedes no lo entienden no lo interiorizan y este gobierno no lo ejecuta así pues este parlamento aunque a veces sea inocuo

pues no deberemos de cejar el empeño muchas gracias eskerrik asko sémper jauna pastor jauna zurea da hitza

no me resulta agradable tener que volver a esta tribuna a volver a hablar de estos temas ni me gustaría tener que haber hecho comentarios con nombres y apellidos de determinados medios de comunicación de uno y otro signo veo que no sería el papel de este parlamento

con su actitud insisto si el lehendakari dijo en esta tribuna

que lo que se había hecho estaba mal hecho que había que corregirlo y que él se comprometía a hacerlo y no lo hace

que a lo mejor no se aplican o a lo mejor no son los correctos porque el resultado viene siendo el mismo que denunciábamos pues evidentemente no se está haciendo lo que se dijo que se iba a hacer porque le quiero recordar otra vez la publicidad institucional no lo dice este parlamentario como establece la ley que la regula no es para ayudar a empresas

de los ciudadanos y de las ciudadanas a información que se considera

y por lo tanto solo hay un criterio fundamental solo uno el número de oyentes de lectores o de televidentes de los medios no cualquier otro que se quiera poner encima de la mesa y para evitar sesgos y abusos

lo mejor es tratar de controlar al máximo posible la discrecionalidad como se hace por cierto la adjudicación de otros contratos públicos que se llevan a cabo

fuera de las campañas institucionales fijar criterios objetivos

que fue el espantajo que nos quisieron poner delante para justificar el desmán que se había hecho en la contratación de campañas institucionales que en ningún sitio ponía que estaban patrocinados se vendían como publicidad del gobierno a través de un medio concreto y en todo caso yo no niego que exista esa figura pero no se puede usar para sortear los criterios de proporcionalidad y de transparencia que es para lo que se quiso usar y por desgracia es por lo que vemos que se sigue poniendo en marcha estos sistemas yo lo que le quería decir simplemente a la señora beitialarrangoitia yo quiero anunciar que vamos a apoyar la propuesta de upyd y la suya también

hacerle un matiz respecto a ese apartado que hablaba de tener en cuenta los medios en euskera que yo entiendo que tienen que estar también recogidos en la publicidad institucional pero

los medios en euskera tienen una ayuda importante extraordinaria que lo criticamos de cuatro coma ocho millónes de euros

para los medios en castellano que tienen una parte de su publicación en euskera

pero se lo pido al partido nacionalista vasco que hagan el esfuerzo máximo porque como le decía a la señora beitialrrangoitia yo usted me puede hablar de que llega al nueve coma cinco al nueve coma nueve

es que reciba más dinero que otro medio que tiene más audiencia o más lectores o más televidentes y cobre más

lo de apropiación indebida de fondos públicos para favorecer a los amigos corrupción corrupción corrupción